gracias presidenta señora consejera le preguntamos

por el futuro de e i te be esta es la interpelación que hemos planteado

y el futuro inmediato de e i te be upyd considera que es una necesidad urgente redimensionar el ente y adecuarlo a los nuevos tiempos en los que la irrupción de internet y las tecnologías digitales

radical respecto a las televisiones y radios convencionales que conocíamos hasta hace muy pocos años si a ello unimos la crisis parece claro que hay que replantearse

radiotelevisión pública nos obliga a decidir qué televisión queremos cuánto estamos dispuestos a pagar cuánto queremos pagar a qué dedicamos nuestros recursos qué dejamos de hacer para financiar la e i te be y qué ofrecemos a los ciudadanos qué podemos y qué queremos ofrecer a los ciudadanos e ir tomando decisiones políticas en esa dirección lo cierto es que desde la creación de e i te be hace treinta años el grupo e i te be ha ido creciendo de una forma en nuestra opinión absolutamente

las cinco emisoras de radio y la empresa de servicios web

estamos hablando en nuestra opinión de un mastodonte de aproximadamente

el pasado año tuvo un presupuesto de explotación de más de ciento sesenta millónes de euros de los cuales casi ciento veinticinco fueron aportados por el gobierno vasco es decir los ciudadanos vascos con nuestros impuestos aportamos al mantenimiento de e i te be

al día es una obligación preguntarse si es razonable destinar tanto dinero para poder ver la televisión o si sería conveniente redimensionar el ente y destinar parte de esa ingente cantidad de dinero a otros asuntos que podríamos considerar insisto mantenimiento del estado de bienestar gasto social sanidad educación etcétera lo cierto es que a día de hoy dedicamos trescientos treinta mil euros diarios para

de e i te be lo cierto es que euskadi tiene la capacidad de decidir a qué destina el dinero de los ciudadanos obviamente y podemos destinar ese dinero a ver la televisión o podemos destinar parte de ese dinero también a otros asuntos esto es lo que

este parlamento y en concreto este gobierno vasco y usted como consejera

e i te be es una especie de símbolo de autogobierno nosotros

mayor interés en que deje de ser un símbolo para determinados grupo políticos pero sí queremos

que sea el mejor instrumento posible para servir mejor a los ciudadanos por tanto no se trata tanto de que sea sino que ofrezca un servicio óptimo para nosotros e i te be tiene que ser un instrumento de comunicación un instrumento de entretenimiento un instrumento de información y el mejor servicio público posible

el necesario redimensionamiento del ente su racionalización su modernización y su remodelación debe ser una decisión política la que decida adecuar e i te be a los nuevos tiempos nosotros defendemos pública pero redimensionada una televisión menos cara una televisión más acorde a lo que realmente necesitamos una televisión sostenible con un presupuesto razonable y adaptada a los nuevos tiempos lo cierto es que la consejera no dijo

en su comparecencia sino más bien todo lo contrario y apenas dedicó un minuto o minuto y medio a este asunto el pasado día quince

en una entrevista radiofónica el máximo responsable del

afirmó que la radiotelevisión vasca tendrá que hacer los ajustes que sean necesarios porque tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias y esta opinión

y también fue el principal causante de su crecimiento del crecimiento de e i te be hasta lo que hoy conocemos y para que quede claro desde el principio

el modelo de ver qué servicio público queremos que preste la radiotelevisión vasca repito lo que ya he defendido varias veces en esta en nuestra opinión solamente hay un servicio público

e i te be que es incuestionable es la emisión

por eso pensamos que no es asumible ningún tipo de privatización del ente porque hay que garantizar la emisión en euskera pero la pregunta es qué hacemos

el ente de modernizarlo de adecuarlo a los nuevos tiempos a nosotros no nos importa nada el reparto de puestos en el consejo de administración de hecho

en el consejo de administración como un paso absolutamente necesario para despolitizar y profesionalizar e i te be pensamos de hecho que los partidos políticos no tendrían que tener representación en ese consejo y que en ese consejo los que deberían estar realmente son los profesionales al margen de los partidos políticos en todo caso nosotros señora consejera le preguntamos qué redimensionamiento va a impulsar en e i te be cómo lo va a hacer va a cerrar canales y emisoras se va a hacer más o menos contratación externa

por la calidad y por le independencia informativa y cómo lo van a hacer en los últimos tiempos han hablado diferentes personas del gobierno vasco incluso el que va a ser el futuro director general de e i te be y

sobre la cuestión hay que pasar a los hechos hay que adecuar la e i te be

nosotros lo propondremos y queremos saber cuál es su opinión muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak

zuk esaten duzu desde su creación hace treinta años el grupo e i te be ha ido creciendo de una forma desmedida hasta alcanzar los actuales seis canales de televisión

y la página web sobre esto la afirmación de que e i te be ha ido creciendo de forma desmedida es una valoración respetable

tal manifestación dirige la crítica al número de canales es decir a la dimensión de la oferta multimedia de e i te be añade usted

de euros de los cuales ciento veinticuatro fueron aportados por el gobierno vasco a esto indicarle que el presupuesto de explotación

sin contabilizar amortizaciones sobre el hecho de que el pasado día quince en una entrevista radiofónica el máximo responsable del pnv afirmó que el ente público radiotelevisión vasca tendrá que hacer los ajustes que sean necesarios porque tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias que según el señor maneiro son las derivadas de la crisis económica y los ajustes presupuestarios se trata de una respuesta a una pregunta de un periodista

exclusivamente en clave de crisis económica y ajustes presupuestarios la afirmación referida

y constato que todas las empresas están realizando ajustes tanto las privadas como las públicas de hecho e i te be lleva tres años en ajustes importantes para controlar principalmente el coste estructural y en relación a ajustes

a la eficiencia y a la productividad en la misma entrevista se hacía referencia a modificar la ley de creación de e i te be para que la elección del director general deje de requerir la mayoría absoluta para pasar a ser simple por aclarar el gobierno vasco ha presentado

sabiendo que debe alcanzar al menos treinta y ocho votos favorables en el parlamento vasco

y no hay ninguna previsión de momento de modificación legal al respecto baina goazen harira

radio euskadi radio vitoria eta lehen aipatutako

nada se ha creado de forma desmedida etb tres y etb k sat se inician con la llegada de la emisión tdt

dos mil nueve ocurrió un hecho importante con la implantación de la tdt si hasta ese momento etb disponía de dos canales de un total de siete es decir un veintiocho por ciento

es decir baja a menos de un diez por ciento beste kate guztiak eitb ren hasieratik datoz edota hamar urte baino gehiago dituzte

komunikazio hedabideetara aitzikitzen zaiona laurogeita hamararen amaieran la conclusión es que el modelo e i te be es singular

con líneas en euskera y castellano desde preescolar a la universidad puede entender usted como problema o como singularidad como coste o como riqueza

determinados trazos gruesos que no hacen justicia a la compleja realidad del país eitb taldearen aurrekontuari buruz hiru ezaugarri dira

oreka esto hace honor al rigor que tiene el sector público en la gestión de sus recursos una excepción dentro de la realidad de los medios de comunicación del estado

por último siempre queda el análisis de coste resultado etb tiene

con resultados mejores a la media en términos de coste hora de sus productos estos análisis son recurrentes

son habitualmente favorables para e i te be asimismo la inversión en e i te be no debemos considerarla como gasto ya que no hace ninguna justicia

e i te be reinvierte y así deberá seguir haciéndolo en el futuro la totalidad de la cuantía de los ingresos públicos en industrias y en empresas vascas

por tanto con retornos de bienes y servicios producto audiovisual con retorno social

en euskera y castellano facilitando la cohesión social fomentando valores sociales y democráticos y finalmente económico compra de bienes y servicios en empresas vascas así como su capacidad para generar un espacio de comunicación propio

sí gracias señora consejera yo no he hablado únicamente de crisis económica ya lo decía al principio que

urgente redimensionar el ente y adecuarlo a los nuevos tiempos

un cambio radical respecto a las televisiones y radios convencionales que conocíamos hasta hace muy pocos años yo he empezado por ahí

económicas en las que nos encontramos la crisis y las estrecheces presupuestarias que lógicamente también habrá que tener en cuenta efectivamente en los últimos dos o tres años ha habido reducciones presupuestarias porque era indispensable llevarlas a cabo ya digo dada la situación económica en la que nos encontramos

esto no es un gasto sino que es una inversión e i te be ofrece un producto lo que hay que valorar es qué producto ofrece y qué parte de estos presupuestos pueden ser considerados como inversión y qué parte de esos presupuestos pueden ser considerados como gasto o qué parte de esos presupuestos pueden ser considerados como servicio público y yo creo que en los tiempos actuales nos sigue pareciendo

un exceso que se destine tanta cantidad de dinero público para e i te be y esta es nuestra posición

a usted lo que le pedimos a su gobierno que concrete cuáles son las medidas que

qué tipo de redimensionamiento va a llevar a cabo a partir de ahora ya digo no solamente por la situación de crisis en la que nos encontramos sino por la necesidad

a los nuevos tiempos y de ofrecer de verdad lo que los ciudadanos necesitan yo también he dicho que consideramos

e i te be que es incuestionable lo he dicho antes que es la emisión en euskera yo no he cuestionado en ningún momento este hecho al revés he dicho esto en concreto que la emisión en euskera es un servicio público que es incuestionable yo le pregunto por todo lo demás

sí pensamos que e i te be ha crecido de manera desmesurada en los últimos tiempos hasta hace

socialista de manera acertada redujo presupuesto usted decía que e i te be ofrece un producto lo que habrá que analizar es qué producto ofrece y la verdad es que e i te be durante años ha estado al servicio de los intereses políticos del partido nacionalista vasco fue una máquina de fabricar nacionalistas

hubo profesionales que trataron de hacer posible que en e i te be hubiera pluralidad

tuvieron ese empeño lo intentaron pero se encontraron con un muro se encontraron en su interior

hace aproximadamente tres años y dada esa situación lo cierto es que el gobierno socialista tiró la toalla

se le impedía impulsar los cambios absolutamente necesarios para que e i te be

un verdadero servicio público a día de hoy e i te be sigue estando tomada por la izquierda

del pnv más allá de que haya también obviamente muy buenos profesionales lo cierto es que desde dentro al gobierno anterior impidieron le impidieron llevar a cabo los cambios que prometieron y a día de hoy no solamente nos encontramos con esa realidad si no con un gobierno que posiblemente no quiera esos cambios en conclusión tienen ustedes dos retos hacer de e i te be una televisión más plural y más profesional y proceder

racionalización que sea un gran servicio público eso es lo que nosotros consideramos por lo tanto queremos saber cuál es su modelo qué proponen exactamente

cierre de canales un redimensionamiento de la plantilla o exactamente qué y en concreto qué presupuestos manejan para

creo que no es demasiado adecuado o útil para el caso de e i te be quizás el término optimización fuera más acertado o ajustado

de que existe en la sociedad vasca un consenso general extenso y duradero absolutamente natural diría

a tenor de sus gestores en sinergias organizativas y en la adaptación de sus productos para favorecer mejor

sí gracias señora presidenta señora consejera buenos días es hace poco más de dos años dos mil diez

y su expansión está siendo espectacular solo durante el año dos mil doce se han destruido

las crónicas a principios del año dos mil doce esta cámara aprobó una iniciativa por unanimidad en la que pedíamos al gobierno que junto con las

elaborase un plan de actuación y de medidas para frenar o hacer frente a este invasor

de dos mil doce los tres jefes de servicios de las diputaciones forales

agricultura del gobierno vasco porque la realidad les estaba sobrepasando y pedían una reunión con las asociaciones de productores y neiker reunión que se celebró el dieciocho de diciembre

estaban trabajando con biodiversidad de gobierno vasco y con el ministerio

planteado fecha límite el quince de enero que es cuando nosotros hacemos esta pregunta y también que coincide con la llegada de un nuevo gobierno

llevar a cabo para hacer frente a esta invasión

apícola solamente sino que también esta especie invasora tiene hábitos muy

es por lo que le pedimos medidas que usted piensa implantar

voy a empezar por decirle que desde luego para este primer ejercicio está previsto realizar una serie de actuaciones consensuadas y debatidas previamente tanto con el sector propiamente como con el resto de administraciones concernidas

ha habido otra más reciente el once de febrero de dos mil trece

como con el sector de apicultores del país vasco y también con el centro de investigación neiker a raíz de esas reuniones

voy a mencionar algunos de los aspectos más concretos se ha acordado desarrollar métodos que garanticen minimizar el efecto de esta avispa asiática desde luego

como en otros posibles sectores que se pueda producir como usted bien hacia referencia en la uva

respetando siempre códigos y aspectos de biodiversidad por eso que estamos trabajando también desde biodiversidad del gobierno vasco

en primer lugar se ha planteado la identificación y sintetización de feronomas que permitan ser utilizadas para atraer a esta

por qué porque de esta forma no afectarán negativamente a otras especies de insectos del entorno algo que sea específico para ellas dado que este objetivo además

más concreta y más a corto plazo investigando la posibilidad de utilizar de forma muy controlada cebos proteicos con biocidas que sean respetuosos con otras

con objeto de poder reducir al menos sino erradicar las poblaciones

entendemos que además necesitamos conocer cómo se distribuye esta avispa con el fin de evaluar dónde se está implantando especialmente caracterizando las zonas de anidamiento y las predicciones que puede tener de expansión a corto medio y largo plazo

por esta plaga que tan rápidamente se está extendiendo por tanto

bueno en primer lugar señora consejera darle las gracias por haberse puesto a trabajar

problemas haciendo referencia a la reunión que hubo el dieciocho de diciembre las diputaciones forales y los representantes sectoriales también plantearon sobre la mesa

seguro que ha previsto esta petición y también si tiene contactos con el ministerio si hay una colaboración

autónomas limítrofes si tiene alguna mesa de trabajo un poco ampliar este campo que yo creo que es importante le agradezco que

de los productores y de neiker porque ha habido administraciones que se han puesto a actuar de una manera independiente y esto ha generado problemas

debate entre productores y administración lo que no es bueno

que esa labor de coordinación se siga fortaleciendo yo creo que va a ser bueno para el sector que estaba sumido en una importante preocupación

esa petición de financiación de determinadas medidas si lo han resuelto o cómo lo están

sí es cierto que hemos acordado también a parte de todas las medidas concretas homogeneización de procedimientos a llevar a cabo en toda la comunidad autónoma por qué porque desde que han aparecido las colonias cada uno de los territorios ha trabajado un poco por su cuenta y de forma independiente por tanto sí lo vamos a hacer a través de un procedimiento único en toda la comunidad pero adaptado a cada uno de los territorios por tanto en función de cómo definamos esa adaptación y demás irá la parte presupuestaria cada uno tendrá que hacer frente a parte

a ayudarlo se trata sin duda de acciones que no vamos a terminar en dos mil trece porque por desgracia me temo que esta plaga va a continuar

que consideramos de la máxima relevancia en este caso mila esker eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua

gracias señora presidenta buenos días bueno ya casi buenas tardes a todos debido

sobre todo en edades más avanzadas el número de personas mayores el porcentaje que estas representan en el conjunto de la población está aumentando más

estos problemas generacionales son comunes en todo europa en españa y por lo tanto también en nuestra comunidad autónoma que no es ajena a ello las personas mayores de sesenta y cinco años representan ya casi el veinte por ciento de nuestra población dos puntos por encima de la media de españa

en nuestra comunidad autónoma se encuentra en ochenta y cinco coma siete años en las mujeres

de las más elevadas de la unión europea evidentemente

y deber considerarse un logro de las políticas sanitarias y del desarrollo económico pero también es un reto

a esta nueva realidad es necesario hacer planteamientos de mejora de salud y de capacidad funcional de las personas mayores así como de incremento de su participación social y su seguridad la importancia de estos retos

el pasado dos mil doce como año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional asimismo el segundo plan de acción internacional sobre envejecimiento incide en la importancia de acabar con estereotipos que invaden el mundo del envejecimiento para evitar una visión negativa de la vejez estereotipos que llevan en ocasiones a que determinadas vulneraciones de derechos que no se tolerarían en ningún caso en otros grupos de población

la asociación equivocada de vejez con enfermedad y dependencia unido a los cambios de estructuras familiares acentuá la vulnerabilidad de los derechos de las personas mayores la falta de autonomía personal motiva una fragilidad que provoca una indefensión que puede ser aprovechada para una merma o privación del ejercicio de los derechos personales sin embargo hay que poner de manifiesto también que un mayor desarrollo de los sistemas de atención social y sanitaria

lo que permitirá actuar para prevenirlas y corregirlas hoy en día aunque falta mucha información al respecto el maltrato a personas mayores constituye una realidad

pero además porque solo se denuncia el diez por ciento de los casos lo son porque en muchas ocasiones las propias personas mayores no son conscientes de lo que esta sucediendo o en otras porque aunque lo sean no quieren denunciarlo ya sea por vergüenza ya sea por no perjudicar a su familia o a sus cuidadores

y es en los años ochenta cuando ya se empieza a utilizar el término de malos tratos a personas mayores

tal y como ponemos de manifiesto en el texto de la interpelación presentada el departamento de empleo y asuntos sociales del gobierno anterior elaboró un estudio sobre prevalencia de malos tratos a personas mayores en la comunidad autónoma del país vasco y vamos a utilizar la definición que utiliza ese estudio la definición más aceptada que ha sido la acuñada por la red internacional para la prevención del maltrato a personas mayores que indica

que el maltrato es cualquier acto único repetido o la falta de medidas apropiadas que se produce dentro de cualquier relación donde hay una expectativa de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor la topología de estos maltratos puede ser físicos psicológicos económicos

o bien la negligencia el abandono o la violación de los derechos básicos además los malos tratos pueden tener lugar en un entorno comunitario doméstico en cuidados de larga duración en la sociedad en general etcétera sin embargo el estudio señala

en el ámbito comunitario porque en el ámbito institucional han tenido más impedimentos para hacerlo en las conclusiones de dicho estudio se establecen en cifras absolutas que existe sospecha

concretamente de sesenta y más años pueden sufrir malos tratos sospecha que es percibida por la propia persona mayor

pero en los que había sospechas de estas conductas de malos tratos casos cifrados en ocho mil doscientos ochenta personas a añadir a los anteriores

casi trece mil supuestos de sospechas de malos tratos a personas mayores arrojó este estudio además

lo que lleva a pensar en una elevada consistencia de dichos datos y dentro de los

en primer lugar están los malos tratos psicológicos seguidos de la negligencia y por último de los malos tratos físicos y sexuales pero como se destaca en dicho estudio

sí que permite disponer de una aproximación orientativa de gran importancia para poder abordar acciones que acaben con este tipo de situaciones es necesario

que generarán resultados positivos en la respuesta comunitaria a este problema la creación de un sistema positivo y en un cambio de actitudes y conductas hacia el envejecimiento con mayor exigencia social hacia el trato que se dispensa a los mayores este estudio creemos que cumplió con su cometido el de acercarnos de forma cuantitativa a esta realidad

protección y puesta en marcha de los mecanismos pertinentes para prevenir y erradicar estas conductas de malos tratos en la propia presentación de este informe que se estableció por la anterior consejera de asuntos sociales la señora zabaleta

acometer tareas de sensibilización y para incorporar

y explicó también que el plan de acción para personas mayores que se iba a llevar a cabo iban a incluir líneas de actuación en este sentido se puso de manifiesto en dicha comparecencia que una vez levantado el velo de esta realidad tocaba intervenir con herramientas eficaces intervención que ella decía que debía y que nosotros consideramos que debe hacerse en colaboración con otras instituciones y con los agentes sociales

bases para un plan de acción se establecían precisamente acciones que debían de realizarse para garantizar el buen trato a las personas mayores y eliminar conductas de

en distintos bloques en el primer bloque en primer lugar estaban las acciones de sensibilización

una prioridad y acciones de sensibilización que estarían incluidas en la prevención primaria y se incluían distintas actuaciones para conseguir este objetivo en un segundo bloque estaría el diseño y puesta en marcha de las intervenciones

prevenir y erradicar estas situaciones son escasas todavía en el documento se recogían propuestas como la creación de un comité de vigilancia contra los malos tratos a personas mayores

implantación de un servicio telefónico de escucha orientación y apoyo a malos tratos y se proponía asimismo que en colaboración con diputaciones y ayuntamientos se creasen oficinas de asesoramiento y atención a personas mayores

promover cambios en el sistema de inspección incorporar sistemas de detección de sospechas de malos tratos asesoramientos especializados o promover la creación de grupos de investigación las actuaciones que llevó a cabo el anterior departamento fue la puesta en marcha de un teléfono gratuito para personas mayores posibles víctimas de malos tratos que pudieran denunciar y que pudieran de esta forma verse apoyadas se llevó a cabo una campaña de sensibilización y prevención de malos tratos consistente en publicidad en marquesinas cuñas de radio anuncios en televisión así como realización de folletos que se repartieron en centros y servicios en los que se atienden a personas mayores pero también se señaló a preguntas

que estas campañas necesitaban continuidad y complementariedad con otras intervenciones tanto en materia de prevención como en la adquisición de competencias sobre buen trato

de su departamento señaló que el envejecimiento activo es una forma de implantar un modelo saludable participativo y libre de dependencias se refirió a las personas mayores pero no concretamente

objeto de esta interpelación y por ello la hemos presentado porque queremos saber cuáles son los propósitos de su departamento en relación con las acciones dirigidas a prevenir y a erradicar estas situaciones

queremos saber si va a partir de ese estudio realizado o va a realizar un estudio nuevo y queremos saber si las líneas que se contenían en ese plan de actuación

en algún otro sitio y en otro tiempo bueno tal y como explica en su justificación conocemos desde hace años estudios como el que se manifiesta en la exposición que refleja la existencia

especialmente además en el ámbito familiar el fenómeno de la violencia que se ejerce contra las mujeres muchas veces de forma trágica ocupa buena parte de la atención pública

no obstante siendo una forma de malos tratos más generalizada no es la única en el ámbito intrafamiliar también los y las menores o las personas mayores sobre todo aquellas que se encuentran en una situación de dependencia son en ocasiones

malos tratos o desamparo en el caso de las personas mayores sobre todo si están en esa situación de dependencia ocurre lo mismo que con los menores de edad pueden tener una mayor dificultad para ejercer la denuncia o para acudir a una instancia intervenir por eso como se dice en la justificación solo tenemos sospechas sobre la cuantificación de esa realidad pero sea en la medida que sea existe y siempre hemos compartido la preocupación por este tema entiendo además que es una preocupación compartida como usted decía con el resto de las instituciones que intervienen en la prestación de servicios sociales destinados a las personas mayores especialmente ayuntamientos mancomunidades y diputaciones forales

son precisamente estas instituciones y entidades quienes tienen una mayor capacidad para detectar muchas veces este tipo de situaciones y también para actuar sobre las mismas de hecho entendemos que ya lo hacen a través de servicios como la ayuda a domicilio los programas de formación y apoyo a personas cuidadoras los centros de día los servicios de inspección de residencias

en nuestro caso en el caso del gobierno vasco es la prestación del servicio de teleasistencia

a las viviendas de miles de familias de miles de personas mayores que están solas o que pasan mucho tiempo solas y que nos permite conocer su realidad concreta

la aportación de los profesionales de la sanidad que como ocurre en el caso de los y las menores pueden detectar posibles casos de maltrato y avisar

o en su caso al ministerio fiscal en cualquier caso es cierto que hay un ámbito al que difícilmente tenemos acceso

el de las familias que no demandan ningún tipo de estos servicios y que pueden resultar escenario de episodios de maltrato hacia esas personas mayores

pueden producirse también casos de maltrato que resulten difíciles de identificar en este sentido siempre hemos mantenido una reserva conceptual

las ayudas por cuidados en el entorno familiar se valora la situación de dependencia se hace un informe social

por eso nos parecen muy importantes algunas iniciativas que están llevando a cabo las diputaciones forales destinadas a visitar y conocer la realidad de esas personas

si realmente quienes las acompañan ejercen adecuadamente esa función cuidadora a partir de ahí en función de nuestras competencias

en los entornos familiares este departamento lleva años desarrollando a través de convenios con la fundación matia políticas de formación

y buen trato a las citadas personas mayores más concretamente en la pasada legislatura el departamento

y a un acuerdo con las diputaciones forales realizó dos estudios sobre esta materia este material se utilizó para la realización de un plan de acción dirigido de personas mayores el primer documento de debate que ha citado usted en su intervención cien propuestas para avanzar en el bienestar y buen trato de las personas que envejecen

en la comisión permanente de mayores el documento constaba

temáticos siendo el último de ellos el titulado

y eliminar los malos tratos incluía ya acciones concretas

la puesta en marcha de un servicio telefónico de escucha orientación y apoyo ante situaciones de malos tratos se realizaron dos campañas de publicidad para hacer socialmente visible el problema y dar a conocer y animar a usar el teléfono gratuito una de las campañas se realizó en el año dos mil once y se habilito el teléfono durante tres meses a través del servicio de teleasistencia así como la campaña publicitaria tuvo su impacto es decir fue percibida

el teléfono apenas tuvo llamadas solo unas decenas la campaña de publicidad se repitió durante el pasado dos mil doce y se habilitó el teléfono

y se ha mantenido operativo hasta el martes de esta misma semana el resultado ha sido aún peor ha habido semanas en las que no ha habido

evaluar el motivo de esta situación la campaña

pero puede ocurrir que siendo socialmente visible no llegue al colectivo al público objetivo aquel que supuestamente es el que esté sufriendo directamente esa situación de maltrato y pudiera además que aunque llegara a ese público

hay que tener en cuenta que se trata de personas mayores y que posiblemente muchas de ellas están en una situación de debilidad de fragilidad como usted decía o de dependencia

de las acciones previstas en el seno de ese convenio de colaboración con la fundación matia para ver cuáles de ellas pueden servir al propósito que estoy convencido

perseguimos lo que sí le puedo avanzar es que en nuestra opinión sería pertinente actuar de la misma manera que se viene haciendo en los casos de los y las menores es decir dotar a las personas que pueden tener relación con ese colectivo

hablamos de médicos de trabajadores sociales de los conocimientos y de las habilidades necesarias para detectar síntomas de que podemos estar

o difusión de folletos y manuales relacionados con el tema de los malos tratos sino directamente a la formulación

de una guía para la detección del maltrato de una guía con un protocolo de actuación

una buena acción en los próximos meses junto con el servicio de la teleasistencia

es lo que más directamente nos compete en función de las competencias que ejerce el gobierno vasco pero como he dicho son los prestadores de servicios sociales de atención directa quienes más posibilidades tienen de descubrir y paliar esas situaciones de maltrato pero como usted bien sabe una cosa es el maltrato físico

a las personas mayores esta segunda parte tiene una dimensión

mucho mayor de una penetración social mucho mayor y mucho menos percibida incluso diríamos que hasta podría estar socialmente aceptada

nos estamos refiriendo a el maltrato o trato poco digno que se da a veces a las personas mayores en el trato diario

en la calle en los medios de comunicación en el debate político por qué no algunas veces o en las propias residencias

existe una tendencia hacia la infantilización de las personas mayores si se me permite la expresión las personas mayores conservan su dignidad intacta

incluso en la situación de mayor dependencia hay en este aspecto algunas experiencias interesantes trabajos en común con medios de comunicación

y todo lo que está relacionado con ellas o también como decíamos y usted también mencionaba manuales de buenas prácticas que incluyen apartados relacionados con este tema

gracias señora presidenta y gracias al señor consejero por sus explicaciones efectivamente usted y yo de este tema

y muy largamente y comparto os lo decía

intervención comparto con usted que mientras que en los malos tratos

cuando hablamos de malos tratos a mujeres que es algo que cada vez es más inadmisible

por hacer pero vamos avanzando sin embargo es cierto que los malos tratos a personas mayores es algo que empezamos en lo que parece que estamos empezando que muchas instituciones están trabajando mucho en ello pero que la sociedad no está absolutamente concienciada de la existencia de estos malos tratos a personas mayores y comparto también con usted cómo decía

menos concienciada con el buen trato a las personas mayores el potenciar que esas personas mayores porque lleguen a una determinada edad

que pueden seguir aportando muchas cosas y que el trato que se les tiene que dar tiene que ser el mismo trato que se les ha dado toda la vida no como usted decía infantilizarlos infantilizar el trato que se les da yo le decía en mi primera intervención y sí me gustaría volvérselo a reiterar que el estudio del que yo extraje estos datos era un estudio de prevalencia y era un estudio que hacía una aproximación porque realmente no hablaba de casos probados que efectivamente es muy difícil es muy difícil ver

estos casos solo hablaba de sospechas por eso yo le preguntaba si desde el departamento se planteaban el llevar

en ese propio estudio de prevalencia y usted lo ha dicho hablaba

de llegar a la confirmación porque para ello es necesario una evaluación mucho más profunda y mucho más pormenorizada de la persona mayor y además en ámbitos y yo coincido con usted que son difíciles de realizar por eso alguna de las cosas que usted ha planteado aquí y que estamos de acuerdo

sobre la procedencia de la prestación a cuidados en el entorno familiar y no tenemos una opinión coincidente sin embargo en lo que sí tengo una opinión coincidente

precisamente para que el cuidado que se realice sea un cuidado adecuado y para que no se den de conductas por eso yo le digo si desde el departamento se plantea llevar a cabo un estudio que vaya más allá de la sospecha aun reconociendo la dificultad de la misma también sí queríamos saber

ha dicho que lo iba a realizar y yo se lo iba a preguntar cuáles son las razones para el fracaso

del teléfono de denuncia y si se han planteado la puesta en marcha

de la misma forma que se hace cuando son las mujeres víctimas de malos tratos que se hace con los menores el incidir no solamente en las personas mayores que también sino también en su entorno

a cabo por el entorno si eso se han planteado y si ese teléfono ustedes se están planteando evaluar las causas para en su caso

desterrado esta idea definitivamente también aunque las ha mencionado pero no le he entendido si va a seguir apostando por esas medidas que se contenían en ese plan en ese documento al que los dos hemos hecho referencia o por contra si va a diseñar estrategias nuevas aunque también es cierto que en este tema las estrategias

bastante comunes en todas las instituciones yo igual que usted digo que cualquiera

es cierto que se tiene que colaborar con las diputaciones con los ayuntamientos con las mancomunidades con las organizaciones del tercer sector y como no con

pero como le decía las acciones a realizar son comunes en casi todas las instituciones de hecho por parte del grupo popular en el congreso de los diputados se ha hecho una petición se ha presentado una proposición para que desde el ministerio se lleven a cabo políticas que van

que es este tipo de actuaciones conjuntas de protocolos de actuación y de que todas las instituciones puedan actuar en una misma eskerrik asko llanos andrea

señora presidenta yo creo que estamos compartiendo el diagnóstico yo creo que el estudio está bien hecho el estudio aporta unos datos que vamos a tener en cuenta y sobre los que ya he anticipado que en estos momentos vamos a hacer esa evaluación de qué ha ocurrido con esta segunda fase en la que ese teléfono no ha funcionado

ocurre a veces que las administraciones ante un problema

la vocación de poner en marcha servicios cuando a veces realmente pueden no ser necesarios no quiero abrir un debate pero

son públicos los estudios que dicen que hay muchos pisos que están vacíos porque todo el conjunto del aparato administrativo fuimos a poner en marcha servicios dedicados a un fin trágico y dramático

ante ese problema se quiso poner una solución rápida que no ha funcionado y aunque le he dicho que vamos a hacer la evaluación me atrevo

que no vamos a continuar con el teléfono y créame a pesar de las enormes dificultades que no se trata de una cuestión presupuestaria sino que creemos ese servicio además de que fueron unas pocas decenas de llamadas algunas o bastantes de ellas no eran

sobre servicios destinados a las personas mayores por eso creemos que hay que establecer o que hay que trabajar en cuatro líneas de actuación

continuar con la fundación matia para seguir trabajando a través del programa etxean ondo y el programa acompaña para detectar

de abordaje de esa situación de malos tratos de las personas mayores en segundo lugar establecer si somos capaces esa guía

y de protocolo de actuación destinado fundamentalmente a los y las profesionales

y del ámbito social tercero utilizar la teleasistencia la teleasistencia nos da una gran penetración en miles de hogares y

se pueden establecer items que sirvan para la detección de esos casos de maltrato a las personas mayores y luego reflexiones conjuntas la prestación para cuidados en el entorno familiar que usted y yo como dice tantas veces hemos debatido

eso que yo suelo llamar poner precio al cariño yo no sé muy bien insisto por qué por cuidar a mi aita o a mi ama

una obligación que tiene que ver con la corresponsabilidad y ese es un concepto que hay que trabajar también el de la corresponsabilidad familiar

intrafamiliar porque yo me atrevería a decir que en alguna medida no la voy a cuantificar

las prestaciones para cuidados en el entorno familiar

en estos tiempos de dificultad en estos tiempos de crisis están sirviendo más que para atender a las personas mayores

no voy a juzgar ese hecho pero sí quisiera ponerlo encima de la mesa por eso hay que estar vigilantes ante esa situación

sin ser seguramente directamente de maltrato sí podría ser calificada como de maltrato económico y seguramente

por eso quiero poner en valor esas iniciativas de las diputaciones forales de algunas de ellas para entrar

cómo se está utilizando esa prestación económica que está costando muchos millónes de euros nada más muchas gracias eskerrik asko

ondorio inportanteak ditu este nuevo criterio de negar la renta de garantía de ingresos a estas personas tiene consecuencias no deseables

y están empadronadas en albergues o centros residenciales para poder acceder a la renta de garantía de ingresos es difícil que puedan salir de la calle en algún momento y acceder a un alquiler o a una pensión y

las personas que están en pisos de inserción o de acogida de forma temporal

con los agentes del tercer sector se nos ha trasladado esta misma preocupación y nosotros interpretamos que la rgi es un instrumento más en el proceso

que se encuentra en una situación de exclusión social y es un proceso de incorporación

y que más tarde quizá pueda ser laboral los itinerarios de inserción contemplan según los casos centros de orientación centros de intervención pisos y en todo ese tránsito la rgi es un apoyo más integrado con el resto

temporalmente dentro de su itinerario necesitan por ejemplo de un alojamiento de un piso de acogida de un albergue ese proceso de incorporación puede

lo que dice este documento que es el que lanbide está trabajando y en este documento no es gratuito porque

del decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil diez el que entre sus requisitos dice no ser usuarias con carácter permanente de recursos de una plaza de servicios entonces los servicios también tienen que aplicar ese servicio

se establece que hay pisos donde el copago es obligatorio y en esos casos el propio documento dice que sí se puede establecer

pero es que además hay un acuerdo firmado entre el gobierno y las tres diputaciones en el año dos mil cuatro que decía que en esos casos entonces la renta básica era posible

que era parte también de ese proceso de incorporación social nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna

bastarrica advierte a bruselas de que lo que está en juego es la vitalidad del euskera

le pedí es que no siguiera adelante con la tramitación del anteproyecto de ley y el motivo es hasta cuándo

y es algo que no deseamos debe respetar las competencias de nuestra comunidad autónoma hasta acordar el respeto con el que se debe tratar el euskara

a través de una fp básica que nos retrotrae a los año setenta hasta acordar que tiene que tener en cuenta las realidades diferenciales

y no solo en cuestión de los objetivos académicos y de rendimiento que propone que por cierto ya están superados en nuestra comunidad hasta acordar su financiación por cierto muy mal calculada

en la comisión mixta de concierto y que no nos puede meter en la misma bolsa de reparto con el resto de las comunidades y todo ello partiendo del rechazo mostrado y manifestado al borrador del anteproyecto por toda una serie de cuestiones que usted señora celaá
yo misma y toda la comunidad educativa plantea y a la que estamos de acuerdo eskerrik asko uriarte andrea

orain hitza sí esta es la primera

y lo hago con toda lealtad institucional y obviamente por la defensa de la educación vasca señora consejera su voz no se ha oído

es una petición que nos deja en una posición claudicante cedente la posición que es la que cabe para una

roto todos los consensos y los acuerdos que teníamos en educación solo puede ser una y es la de la retirada además

es el oportuno es un momento procesal en el que todavía estamos en fase de anteproyecto ni siquiera ha entrado por el consejo de ministros ni siquiera no queremos lo que está proponiendo el ministro wert y no queremos

mucho antes de que puedan desarrollar sus destrezas no queremos que ahorre en la eliminación de los profesores y gaste sin embargo en reválidas

que elimine el tratamiento de refuerzo para gastar en pruebas de acceso

con amnesia económica porque dice la administración general del estado que va a trasladar cuatrocientos millónes para implantar esa ley cuando nos acaba de retirar cuatro mil millónes de euros de la educación española en este caso y la educación vasca

no necesita para nada la aplicación de la

y usted tiene que mantener una posición de firmeza es el momento de unir nuestras voces como comunidad la suya como representante de esta comunidad en educación a las voces de progreso en la defensa de la educación precisamente no regresiva

han sido aún más reaccionarias léase la religión y su alternativa

no queremos eso y señora precisamente eso es lo que yo le estoy pidiendo a usted una posición firme

queremos un esfuerzo importante una voz clarísima en la defensa del sistema educativo vasco y contra

eta jarrera irmo dauka gobernu honek quiero dejar claro que nuestra postura firme es una postura firme por cierto es de diálogo permanente negociación bilateral negociación parlamentaria y todo aquello que esté en nuestra mano eta lanean jarraituko dugu

todo suma hay camino que recorrer y hay que utilizar todos los medios ya habrá tiempo si el diálogo no da sus frutos ya habrá tiempo de tomar medidas más contundentes denok guztiok

vamos a coincidir en algunos de los planteamientos y en otros menos pero bueno como ustedes saben onkologikoa el instituto oncológico de kutxa y como

es un centro monográfico de prevención diagnóstico y tratamiento del cáncer en el que trabajan hoy en día más de trescientos profesionales la mayoría oncólogos cirujanos farmacéuticos

una combinación de profesionales indispensable para abordar una enfermedad como el cáncer desde una perspectiva multidisciplinar y fundamentada en el trabajo en equipo a través de profesionales con conocimientos habilidades y experiencias onkologikoa lleva dando tiempo servicio a pacientes de gipuzkoa y otros territorios de euskadi

mediante los conciertos suscritos y renovados periódicamente ahora con el departamento de salud antes con el departamento de sanidad del gobierno vasco aparte de estos conciertos

en el año dos mil diez kutxa la propietaria del onkologikoa

fundación onkologikoa bajo un patronato

dispone de setenta y cinco camas cuatro quirófanos un radioquirófano una unidad de reanimación postoperatoria un hospital de día veinticuatro salas de consultas dos salas de endoscopia

etcétera una dotación tecnológica francamente buena los servicios se encuentran actualmente en un edificio

y que como muestra clara de la kutxa es nuevo desde el año dos mil nueve

por lo tanto una proximidad y una accesibilidad excelente para colaborar

la kutxa tuvo en ese momento una inversión de sesenta y dos millónes de euros

de salud ha sido importante y sostenida en el tiempo

y el papel que se le ha asignado en la estrategia oncológica de euskadi y en especial de gipuzkoa así el año pasado ha registrado

sesiones de quimioterapia más de siete mil quinientos sesiones de radioterapia

la mayoría de ellos para el programa de detección precoz del cáncer de mama del departamento de salud por citar la actividad más relevante además hay prestaciones

es en gipuzkoa la referencia para el sistema sanitario público vasco

de no duplicar servicios especialmente en aquellas prestaciones de alta complejidad tal como expresamos

la comisión de salud y consumo de este parlamento nuestro interés va a ser

muy importante con este centro y dotarle de la mayor estabilidad posible por otra parte es también de interés conocer la complementariedad

y el onkologiko dado que entre ambos disponen una cartera de servicios muy completa para el abordaje de la atención oncológica

también se puede considerar referente en alguna de las prestaciones y de hecho el onkologiko

tomoterapia y radiocirugía y al hospital universitario de donosti entre otras prestaciones que pueda tener compartidas

para determinadas cirugías oncológicas y muy claramente

pero esta complementariedad entendemos no es incompatible con la naturaleza pública del hospital universitario de donosti y la privada del onkologikoa pese a que es un centro concertado y por nuestra parte lo consideramos integrado

la naturaleza del onkologiko es una naturaleza privada de hecho

y nuestra responsabilidad debe ser aprovechar los recursos existentes en el sistema sanitario máxime en un tiempo de crisis para garantizar una atención pública y de calidad tenemos áreas de mejora cómo no como en todas las situaciones en las que dos organizaciones independientes prestan servicios de manera complementaria y vamos a intentar avanzar

y de euskadi es voluntad de este departamento de salud trabajar con ambos centros

en un entorno claro de colaboración y que tenga como punto fundamental el reconocimiento de su interdependencia funcional en esta línea de trabajo el último trimestre del año pasado se creó un grupo de trabajo con profesionales de las dos organizaciones y del departamento de salud que tenemos voluntad de mantener

analizar áreas de mejora e incrementar la calidad de atención oncológica que puedan prestar ambos centros señora ubera compartimos su visión

para el sistema sanitario vasco compartimos que es un centro de prestigio en euskadi y compartimos

y tiene un papel relevante prestando servicios sanitarios de calidad en el ámbito de la oncología a través del concierto que mantenemos con ellos en enero de este mismo año a escasas tres semanas de mi toma de posesión mantengo una reunión con representantes de la kutxa

para valorar la situación del oncológico incluso antes de que se produjera las

dado que el convenio entre ese centro y el de departamento de salud

les trasmitimos nuestra voluntad clara de firmar un concierto

económica y asistencial y este va a ser nuestro objetivo estamos ya valorando las prestaciones que ofrece actualmente oncológico y estamos valorando el conjunto de atención oncológica de gipuzkoa para sin prejuicios y sin prejuicio de los servicios

podemos ampliar nuestra colaboración con el oncológico no queremos ni buscamos desentendernos del futuro del oncológico somos conscientes

y compartimos que presten atención sanitaria oncológica de calidad

ahora no debemos olvidar que se trata de un centro propiedad de la kutxa es un centro privado que forma parte de su obra social

corresponde a su patronato y a los gestores por él designados y corresponde al departamento de salud

de los pacientes que son atendidos en el concierto vigente

señora ubera el oncológico forma parte de la obra social

vamos a apoyar al oncológico la prueba que tiene usted del liderazgo del gobierno y el compromiso con el oncológico es que antes de esta comparecencia el trece de febrero

de la obra social participar como gobierno y como departamento de salud

y desde el trece de febrero tenemos al viceconsejero formando parte del patronato
ese es el liderazgo que vamos a aportar nosotros al oncológico eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

are gehiago ingurumenaren errespetua eta beharrezko gizarte adostasuna gehituz y siguiendo esos criterios que esperamos se nos sigan detallando se nos sigan

de esa mera definición concluimos por lo que usted ha dicho que su departamento considera innecesarios contraproducentes diríamos nosotros pero en todo caso innecesarios

consideración que para con esos dos proyectos nuestro grupo comparte lo que no sabemos es si el grupo que soporta la acción de gobierno y digo soporta sin ningún tipo de lectura

de la que señala la palabra también mantiene en ambos casos tanto usted como el partido nacionalista vasco hablan de proyectos estratégicos señalan

pero llegan a conclusiones diferentes lo que para usted es un proyecto que no es prioritario y por lo tanto no es estratégico sí aparecía en algún caso concreto fundamentalmente el del puerto exterior de pasaia como estratégico para el partido que apoya la acción de gobierno

apoyamos su decisión de no seguir adelante con el proyecto de metro de donostialdea

desde dos perspectivas diferentes siguiendo dos lógicas diferentes pero creemos igualmente que tampoco existen razones objetivas que avalen la obstinación o el empeño

en seguir adelante con el tren de alta velocidad porque cuál era el contexto en el que se pensó y se soñó por parte de algunos

un contexto marcado por la eclosión de proyectos faraónicos ligados a una realidad pasada que tenía que ver con un desarrollismo brutal que no tenía freno

de determinadas empresas y con intereses desde luego muy perecederos de una determinada parte de la sociedad y con un consumismo inducido que pretendía que aquello que se construía

a esa consumo en definitiva una prioridad del dinero

pero también había un contexto de interpretación que tenía que ver con una lectura de los territorios al servicio de una economía global esa todavía hoy se mantiene a raíz de lo que pudimos ver en el debate

que no desertizara zonas que diera respuesta a la demanda de transporte que realmente tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas que en un noventa por ciento

un recorrido intra un recorrido dentro de la comunidad autónoma vasca y que no depende no exige esa inversión brutal que se quiere hacer con el proyecto

o el capitalismo sirviéndose de la ecología y el ecosocialismo y probablemente esa sea la lógica diferente que mantenemos lo verde como oportunidad de negocio o lo verde como principio a la hora de entender o abordar cualquier negocio

señalaba usted en la comparecencia que para usted era prioritaria las personas frente al medio ambiente mientras que para nosotros

yo creo que no es así yo creo que la biomímesis resuelve muy bien esa disyuntiva que usted plantea es decir las personas somos parte de un ecosistema cuando nosotros hablamos del medio ambiente del medio natural como eje central

sobre el medio ambiente porque nosotros sí tenemos la capacidad de influir en él de determinarlo y ahí están cumbres como la del cambio climático y otras que nos señalan la certeza y la certidumbre de esos planteamientos por tanto

una diferencia fundamental la de la prioridad en las personas o en la acción para y por las personas la que nos diferenciaba pero en cualquier caso lo que sí que veíamos y vemos todavía es la apuesta por un crecimiento ilimitado frente a un decrecimiento sectorial porque si

lo que no entendemos es por qué los límites de crecimiento no han de ajustarse a esa realidad finita y se siguen planteando en lógicas de desarrollo que no contemplan el carácter finito

erkidegoko herritar guztion dirua eta baliabideak aurreratuz sí porque se plantea el adelanto de recursos propios recursos de la comunidad autónoma vasca para seguir construyendo el tav en este caso en el ramal guipuzcoano

a adelantar más dinero de los vascos y de las vascas para poder acometer la parálisis en la que se encontraban algunos tramos del ramal vizcaíno pero como decía fundamentalmente ahora se centran ese adelante

al ramal guipuzcoano a ese territorio rojo del este como señaló ayer josé luís bilbao y que debo reconocerle que me disgusta

zertarako esan dudan bezala norabide gabeko trena porque creemos que adelantar trescientos cincuenta millónes de euros como hemos señalado y por mucho que se nos diga que es un dinero que

cómo es vinculado esa reflexión del dinero no gastado con la deuda de ochocientos millónes de euros que parece que el estado sostiene y mantiene con nosotros vía cupo si nosotros adelantamos el dinero y a nosotros nos deben ochocientos cincuenta millónes de euros

no salen y por tanto hay un dinero que podríamos no gastar o que podríamos gastar en otras cosas

porque es un proyecto que parte de ningún lugar y nos lleva a ninguna parte usted señora consejera en la comisión en la que compareció señaló la parálisis actual del tramo burgos vitoria salvo que el tren contemple

que a mí se me escapa a través del trazado ferroviario no sé para cuando va a ser posible conectar a la y vasca con madrid que era uno

de dicha infraestructura en este país nuestra posibilidad de desplazarnos a madrid y de hacerlo en un tiempo muy corto razonablemente mucho más corto que el que se garantiza por carretera y casi casi competitivo

prevista como usted señaló para el dos mil dieciocho no tienen previsto acometer la ejecución del trazado

luego probablemente hasta el dos mil veintidós dos mil veintitrés no será posible viajar desde bilbao gasteiz o donostia hasta madrid en tren de alta velocidad debemos concluir eso es

rentable a esa infraestructura pero le decía también todo esto a la vez que vemos como se nos explica y se nos detalla la necesidad de acometer recortes en sanidad recortes en educación

se presentan como una inexcusable verdad a la que hay que

nosotros insistimos en la necesidad de que se replantee también el carácter estratégico de este proyecto a que dentro de esa lógica interpretación de lo que es estratégico y prioritario y lo que no es en función de los detalles de atención a criterios medio ambientales ecológicos económicos y de rentabilidad social se de alguna manera la revisión del tren de alta velocidad y podamos hacer el debate social que este país necesita para saber qué es lo que este país y sus ciudadanos y ciudadanas necesitan en definitiva

a un derroche de dinero que contribuye a un expolio que hoy en día a través del cupo y de la negación siquiera a completar el conjunto de lo que se le debe a la ciudadanía vasca a través del cupo

legebiltzarkideok egun on vivimos en un territorio densamente poblado con una de las densidades urbanas mayores de europa y en este contexto

en particular son elementos necesarios para la convivencia el empleo

y la mejora de la competitividad en suma para un territorio equilibrado y sostenible y para mejorar también la calidad de vida de la ciudadanía en un momento como en el que nos encontramos y siendo absolutamente concientes de la realidad económica

actuaremos con responsabilidad con responsabilidad analizando todos los proyectos pendientes y además estableciendo prioridades efectivamente

rentabilidad social y rentabilidad económica no

y procesos de concertación necesarios realizados y por supuesto no iniciaremos obras que no tengan las garantías presupuestarias

sí señalar que nos preocupa que se plantee que actuarán con responsabilidad algo que no vamos a poner en duda

no se vea sometido a todas esas exigencias de responsabilidad

decir que no nos sentimos respondidos con el desglose que le pedíamos sobre cuáles son los criterios que determinan el carácter estratégico

cómo se mide y en qué se mide el acuerdo interinstitucional y ciudadano cómo se mide y en qué se mide y finalmente el respeto medioambiental cómo se mide y en qué se mide

señor matute creo que de manera parca es cierto pero

a la interpelación que usted mandó a nuestro departamento a través de la mesa del parlamento vasco donde nos preguntaba qué criterios utilizará el gobierno vasco a la hora de determinar que unas infraestructuras son faraónicas o innecesarias

porque no era el objeto de esta interpelación en concreto el tren de alta velocidad teníamos alguna otra pregunta pero ha sido retirada

en ese sentido decir y reincidir en lo que ya he dicho en la primera intervención que no vamos a iniciar ninguna obra que no tenga las garantías suficientes para su terminación

y con todos los trámites y con todas las autorizaciones necesarias disponibles por tanto creo que he

así continuaremos llevando a cabo en colaboración con las administraciones locales concernidas las actuaciones recogidas en los planes de prevención de inundaciones y en particular